hemos solicitado este pleno monográfico sobre fiscalidad porque

para todos aquellos que defendemos la igualdad la solidaridad y la justicia social y para aquellos que queremos con esas bases construir una sociedad decente en la que ningún ciudadano o ciudadana se quede abandonado a su suerte

sin una fiscalidad justa y la nuestra no lo es no es justa porque tenemos un sistema fiscal que está sustentado fundamentalmente

y eso es injusto es un sistema fiscal en el que los trabajadores pagan mucho más hasta un cuarenta por ciento más de media que los profesionales liberales y eso es injusto es un sistema fiscal

buscar mil vericuetos para pagar mucho menos de lo que les corresponde y eso es injusto es un sistema en el que las rentas de capital pagan mucho menos que las rentas de trabajo una persona que cobra mil quinientos euros al mes el veintitrés por ciento en el irpf y alguien que gane uno millón de euros en dividendos paga menos un veintidós por ciento y eso es

de quienes escapan sin pagar la ronda y esto no lo digo yo lo dice un informe de la universidad del país vasco y eso es injusto por eso tenemos que cambiarlo

que a las derechas les gusta mucho plantear la fiscalidad como una especie de expolio insaciable de los recursos personales de la gente

para intentar reducir a la mínima expresión los impuestos

diciendo que los ciudadanos saben utilizar mejor que las administraciones su dinero y que lo hacen de forma más eficaz

se ha repetido en tantas ocasiones pero lo malo de esta visión de la fiscalidad el de un recaudador sin alma que va arrancando los ahorros

es que legitima la resistencia y legitima el fraude fiscal porque con este argumento lo que se trasmite es que se intente y que se busquen las fórmulas para pagar lo menos posible y utilizar todas las vías a nuestro alcance para poder hacerlo pues por el contrario para los socialistas

es herramienta de solidaridad es el instrumento con el que llevamos a la práctica el ser miembros de una sociedad en la que gestionamos de forma conjunta el progreso

una sociedad en la que se reparten las cargas según las posibilidades de cada uno y se redistribuyen los recursos según las necesidades de cada uno para eso sirve la fiscalidad esto no es

una carrera alocada para subir o bajar impuestos según las apreturas del momento o según las apetencias del gobierno de turno no la fiscalidad es una de las bases fundamentales sobre las que construir país y construir sociedad si ustedes quieren medir

de una sociedad el nivel de apoyo mutuo y de solidaridad miren su fiscalidad

el nivel de su fraude fiscal la fiscalidad es el espejo de la moralidad social es el reflejo de la ética ciudadana y cumple tres objetivos dotar de recursos para el mantenimiento de los servicios y de las prestaciones públicas es decir

redistribuir la riqueza entre la población es decir actuar con justicia social e impulsar la modernización

de la economía es decir buscar el progreso colectivo casi nada igualdad solidaridad justicia social y progreso colectivo

los socialistas no queremos tener servicios públicos para hacer una administración enorme y derrochar el dinero de la ciudadanía no queremos servicios públicos

ante la vida y ante la enfermedad y son la garantía de la dignidad de la ciudadanía y para tenerlos para sostenerlos

públicos suficientes hace falta recaudar de forma justa esta es una de las funciones de la fiscalidad aportar recursos

no condicionen irremisiblemente el futuro de nadie para que las desigualdades de la cuna

de todas las desigualdades y los socialistas defendemos que cualquier persona haya nacido donde haya nacido pueda llegar

de universidad pueda poner en marcha su propia empresa ser un científico excelente queremos que cualquier hijo o hija de un trabajador pueda ser lo que con su iniciativa y su esfuerzo quiera ser

ni una cuestión menor este es el significado último de los servicios públicos de la educación de la sanidad de las políticas sociales por eso

les quiero decir que cuando una sociedad recorta servicios públicos

margina a las personas en la carrera de la vida para dar ventaja a los pudientes eso es lo que pasa cuando se enarbola la bandera

que solo acaban teniendo acceso a la cobertura de sus necesidades quienes pueden pagárselo y esto desde luego los socialistas no

porque es un determinante básico para procurar la cohesión social lo más importante que puede tener un país la cohesión

una fiscalidad que nos procure recursos suficientes para sostener los servicios públicos y las políticas públicas pero la fiscalidad no solo provee de recursos a los servicios públicos la fiscalidad progresiva

de redistribución de la riqueza los socialistas creemos en la iniciativa de las personas sí pero defendemos que en una sociedad mínimamente digna y cohesionada la desigualdad tiene que tener

materiales por eso defendemos mecanismos automáticos de redistribución de la renta a eso se le llama fiscalidad progresiva que aporte más quien más tiene esto para algunos antes era una ocurrencia hoy parece que no que aporte más

se ha ido reduciendo en la medida en que los impuestos indirectos han ido creciendo en importancia los impuestos indirectos que pagamos todos no discriminan

de las posibilidades de cada uno y esto no es justo y esa es una tendencia que tenemos que corregir para no perder de manera definitiva el elemento de justicia social que encierra también

la fiscalidad y por último la fiscalidad debe garantizar el impulso a nuestra economía y ayudar al crecimiento

que dicen que el impuesto de sociedades impide crecer a la economía que resta competitividad a las empresas y que si se reduce o se elimina las empresas y los empresarios crearán más empleo bueno pues esto es radicalmente falso esto no es verdad

lo que le corresponde porque el impuesto de sociedades es un impuesto sobre el beneficio empresarial sobre el beneficio y por lo tanto

los costes de producción solo se paga si hay beneficios qué eso reduce el margen de ganancias claro

el margen de renta personal pero dónde está la maldad del impuesto de sociedades simplemente en que algunos no quieren pagar nada de los beneficios

en qué afecta a la competitividad en nada absolutamente en nada sobre todo porque es que además ya sabemos también el tipo real al que se pagan esos beneficios gracias a las deducciones

se paga a la mitad o menos de la mitad del tipo nominal y precisamente esto es lo que los socialistas queremos que se revise nos parece bien que haya bonificaciones incluso exenciones cuando se considere necesario pero siempre que se apliquen

sino exclusivamente a aquellos que reinvierten parte de sus beneficios en la propia empresa bien sea en innovación en desarrollo para aumentar la productividad y la competitividad

creando puestos de trabajo el resto tendrán que pagar todo

sin rebajas de ningún tipo como todo el mundo y por cierto los socialistas pedimos

por lo menos un punto para las pymes que son las que están haciendo el mayor esfuerzo en este país y es que les puedo asegurar que no queremos

para detraer recursos a la economía vasca lo queremos

y por eso planteamos también algo que decían ayer los empresarios queremos utilizar este impuesto sobre los beneficios de las empresas para invertir en la economía y para crear empleo convertir lo que obtengamos

de las bonificaciones y de las exenciones en recursos para ayudar a nuestras empresas no queremos esquimar nada y como sé que alguno me replicará eso hombre ya lo hacen mejor los empresarios a su aire les diré

una verdad a medias y por lo tanto muy peligrosa porque los empresarios son buenos empresarios o pueden ser buenos empresarios en la medida en la que tienen trabajadores bien formados en la medida

acumula suficientes sinergias de conocimiento y de iniciativa para crear nuevos proyectos y eso los empresarios solos no lo pueden hacer

porque estamos hablando de inversiones de país de las que se hacen con los recursos públicos de todos y de las que luego nos beneficiamos todos

y para eso necesitamos recursos para eso queremos también una fiscalidad suficiente para ayudar a la economía para ayudar a las empresas para ayudar al empleo y crear las condiciones necesarias para ser más competitivos en un entorno global

atendiendo a todo esto que acabo de decir queda claro que el debate sobre fiscalidad no es como siempre han pretendido hacerlo aparecer algunos

sobre el país que queremos y sobre cómo lo hacemos

el debate de la fiscalidad por eso llevo más de tres años planteando la necesidad de una reforma fiscal en euskadi

luego se me criticó y más tarde se dijo que no podía ser pero la verdad es que hoy

puede gobernar sin hablar de la reforma fiscal y todo el mundo ya habla de ella aunque sea a rastras aunque sea de mala gana bienvenidos a la reforma fiscal nos deben como mínimo tres años tres años de tener menos recursos tres años de ser injustos en este país tres años de mermar nuestra capacidad para combatir

hoy por otra voluntad en todos los grupos hemos traído este debate aquí

aquí donde estamos todos y todas porque queremos que sea esta cámara la que lidere y la que decida esta reforma porque el parlamento que representa al conjunto de euskadi es el lugar

un asunto que nos afecta a todos los vascos y a todas ya sé que algunos levantarán la voz para decir que no que no se puede que este no es el órgano competente bueno pues ya está bien sí este parlamento es el órgano competente este parlamento tiene las suficientes competencias

y las directrices comunes para la fiscalidad de los tres territorios y las tiene porque así lo establecen las normas básicas de nuestro autogobierno lo que pasa es que algunos se han puesto las gafas de ese foralismo intangible

y durante demasiados años nos han impuesto una única interpretación la que más le conviene la suya he tenido que escuchar muchas veces demasiadas que en esta cámara no se puede hablar de fiscalidad que de impuestos y de fraude fiscal solo se puede hablar o solo pueden tratarse en los órganos de los territorios lo han repetido tantas veces durante tanto tiempo que mucha gente se ha creído que es así que este parlamento no tiene nada que decir

han estado cometiendo fraude a la ciudadanía vasca arrebatando a este parlamento decisiones que le correspondían legítimamente y adoptando otras de manera nada transparente en lugar de decidir la fiscalidad aquí

siempre la han decidido en unos pocos despachos y de espaldas a todo el mundo pero yo quiero reivindicar esta cámara

nuestra norma fundamental lo que leo es

que dice las instituciones competentes de los territorios históricos podrán mantener establecer y regular dentro de su territorio el régimen tributario

se contengan en el propio concierto y a las que dicte el parlamento vasco para idénticas finalidades dentro de la comunidad autónoma cuando

y leo el apartado cuarto de su artículo tres el de los principios generales dice textualmente o habla textualmente de coordinación armonización fiscal y colaboración mutua entre las

dicte el parlamento vasco y lo mismo señala

sacrosanta ley de territorios históricos dice que el parlamento vasco

de establecer el marco de coordinación de armonización de colaboración en el que las diputaciones y las juntas generales deben ejercer sus capacidades tributarias y esto también es lo que se desarrolla en la ley que esta cámara aprobó el treinta de mayo de mil novecientos ochenta y nueve

finalidad por lo tanto lo incoherente y diré lo alegal es lo contrario el cuento que nos han impuesto

ni nada que decir en un asunto vital para toda la ciudadanía vasca y así nos encontramos con que casi veinticinco años después de su aprobación la ley de armonización coordinación y colaboración fiscal está prácticamente virgen nos encontramos con que tenemos un órgano de coordinación tributario

pero nos encontramos también con que seguimos por ejemplo sin tener planes de inspección conjuntos para las haciendas forales como obliga la ley

de sus servicios tributarios artículos catorce y quince siguen sin estar conectados

con más eficacia contra los que defraudan y ha sido así no por fatalidad no por que los parlamentarios vascos que aprobaron estas normas no supieran lo que hacía si no porque el pnv ha vaciado

estas normas por cierto ahora con la colaboración del partido popular porque de armonizar aunque mal y de forma ilegítima ya se ocupaba

por eso no es cierto como se ha dicho que yo pretendiera desde el gobierno arrebatar las competencias que correspondan a los órganos de los territorios no al contrario lo que ha habido es algunos

las decisiones que corresponden al parlamento de euskadi y por eso me felicito de que se celebre este pleno monográfico porque estamos hablando aquí

estoy convencido ya de que nada va a ser igual en esta materia a como ha sido hasta ahora tampoco por ejemplo va a ser igual en una cuestión sangrante que necesita de medidas y actuaciones mucho más decididas de las que se han puesto en marcha hasta ahora

porque la reforma fiscal con ser muy urgente y necesaria no es suficiente por sí misma la mayor quiebra de justicia y de igualdad ante la ley

en el fraude fiscal y lo tenemos que decir con claridad en euskadi tenemos demasiado fraude fiscal y no vale

cualquier nivel de fraude es demasiado y el que tenemos en el país vasco es demasiado puede que a alguno no le guste lo que voy a decir pero en euskadi ya sé que en otras partes también pero a mí me importa esto en euskadi tenemos un problema social

no se trata ya de que un grupo defrauda es un problema que ha echado raíces en buena parte del entramado social hay empresarios que defraudan

hay empresarios que defraudan y que además llevan su dinero a paraísos fiscales la semana pasada nos enteramos

unos billetes que venían de suiza y que eran de ciudadanos vascos que querían recuperar

hay profesionales y autónomos que defraudan sí hay

no puede ser lo decía antes no puede ser que la media de la renta declarada por los profesionales y por muchos empresarios sea un cuarenta por ciento menor que la de sus asalariados

en estas declaraciones tenemos ciudadanos o ciudadanas que defraudan sí también desgraciadamente tenemos una sociedad permisiva en ese sentido

bueno por eso tenemos que plantear una rebelión moral ciudadana

y sé que es un problema complejo sé que no se arregla en un día que requiere de políticas públicas continuadas y de la modificación de actitudes sociales pero se tiene y se debe de hacer no podemos pedir sacrificios

en la oscuridad del fraude fiscal por eso propongo y reclamo seriamente

un plan de lucha contra el fraude coordinado conjunto y único para toda euskadi una lucha que debe sobre tres ejes educación a la ciudadanía para cambiar hábitos y actitudes modificación de la normativa para dificultar el fraude

y un sistema de inspección más eficaz que sea implacable con los defraudadores tenemos que hacer un esfuerzo de mejorar el sistema de inspección tributaria

de inspectores mejorando el uso de las herramientas informáticas y compartiendo la información en tiempo real de las tres haciendas vascas

un único y conjunto plan de lucha contra el fraude para toda euskadi que sea liderado por el gobierno vasco en colaboración con las tres diputaciones invertir en la lucha contra el fraude no solo es un gasto necesario

una inversión ética de país y termino planteando los criterios generales para una reforma fiscal más justa y suficiente las concreciones ya vendrán a la tarde con la presentación de nuestras resoluciones primero una fiscalidad más simple

en nuestra normativa fiscal hay demasiada letra pequeña

que abren la puerta a la elusión de las personas que pueden permitirse un buen asesoramiento

menos igualdad ante la norma más posibilidades

puedan eludir el pago de lo que le corresponde y nuestra obligación es simplificar al máximo toda la normativa

esos casos y sobre todo para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda saber el qué y el por qué de sus impuestos segundo revisar el gasto fiscal

lo que se deja de recaudar aunque sea por vericuetos legales es otra forma de gasto público pero es un gasto sin control y mientras discutimos aquí en este parlamento a veces de manera vehemente cada partida presupuestaria de veinte mil euros de diez mil de dos mil

a nuestro control porque lo decía antes dejamos de recaudar con exenciones con bonificaciones que en muchos casos no los objetivos para los que fueron creados y que en otros casos solo sirven

y tenemos que analizar todas las exenciones y bonificaciones para mantener solo las que cumplen los objetivos pretendidos y para que tengan un control

solo suponen otra forma de fraude tercero equiparar las rentas de capital y las de trabajo antes ponía un claro ejemplo un trabajador que gana mil quinientos euros paga un veintitrés por ciento del irpf

esto no se puede sostener y esto hay que cambiarlo sí o sí cuarto equiparar las rentas de empresas que no tienen actividad real

crear empresas tapadera para que así no haya quien pueda derivar su patrimonio sus actividades económicas a estas empresas solo con el objetivo de pagar menos impuestos tenemos que acabar con esa fórmula que llevó a decir no sé si fue a un gobernador del banco de españa aquello de

y cada vez tengo más amigos que son personas jurídicas hay que acabar con esto y esto solo se consigue exigiendo que empresas sin actividad económica sin facturación tengan un tratamiento fiscal igual a las rentas de trabajo antes a esto se le llamaba transparencia fiscal

no es así y tenemos que recuperar esa figura para estos casos

quinto aumentar la progresividad en los tramos altos de las rentas esta es una cuestión además de justicia

en momentos de crisis porque se han cargado las consecuencias de la crisis en las espaldas de los funcionarios de los trabajadores de los pensionistas de los parados bueno pues creo que corresponde y que es nuestra obligación que quien más tiene también aporte más

que a todos nos toca en esta crisis y en este sentido sexto

anticrisis sí que hagamos efectiva a través de subidas temporales de algunos impuestos esa cuota de corresponsabilidad a los que más tienen a las rentas más altas

patrimonios bueno estos son los principios que inspiran las propuestas concretas que mi grupo va a presentar en sus resoluciones de esta tarde y quiero terminar

que mi grupo parlamentario presentará durante este ejercicio una proposición de ley para armonizar de forma efectiva la fiscalidad vasca y definir los criterios básicos que deberán aplicarse en su desarrollo en los territorios una propuesta en la que este parlamento establezca los elementos sustanciales de los impuestos comunes el hecho imponible la base las tarifas de los impuestos las deducciones un mínimo común aplicable al conjunto de los tres territorios

debe hacerse realidad también en nuestro sistema fiscal no tiene ningún sentido que una empresa por ejemplo de ermua tribute a un tipo mayor que una de eibar que está solo quinientos metros y que pertenece al mismo sector qué país es este

de poco más de dos millónes de personas y no podemos mantener semejantes diferencias en los impuestos que pagamos no podemos permitirnos semejantes desigualdades

este pleno monográfico debe ser la primera piedra para avanzar hacía una fiscalidad vasca común coordinada y más justa y la propuesta que traeremos

tres años hemos tardado en que todos coincidan en la defensa de la reforma fiscal esperemos que tarden menos en la necesidad de su armonización
en la necesidad de construir un país de iguales eskerrik asko eskerrik asko lópez jauna gainerako

gracias presidenta buenos días a todos señores consejeros señor lehendakari buenos días upyd como todos ustedes saben siempre se ha mostrado dispuesta a debatir en este parlamento sobre fiscalidad de hecho pensamos que es el órgano adecuado para hacerlo

y transparencia de hecho así lo hicimos durante la pasada legislatura y lo hacemos y lo haremos en esta siempre que sea necesario

no solamente ahora en euskadi sino que también tenía que haber sido en el pasado así varias han sido las ocasiones durante la pasada legislatura en las que upyd

debates como cuando ya en diciembre del año dos mil nueve señor lópez planteamos la necesidad de recuperar el impuesto sobre el patrimonio en álava y en bizkaia suprimir las icap

pedir progresividad en aquella famosa deducción lineal del de los cuatrocientos euros o defender un mayor compromiso en la lucha contra el fraude fiscal finalmente

señor lópez señores parlamentarios en diciembre del año dos mil nueve upyd se quedó sola junto con ezker batua

y el incremento de medios para la inspección fiscal diciembre del año dos mil nueve pnv y pp

del año dos mil nueve salió aprobada una transaccional acordada por el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco que en aquellos tiempos las mismas ideas en materia fiscal en diciembre del año dos mil nueve señor lópez el grupo socialista firmó una transaccional con el grupo nacionalistas vascos para defender la misma fiscalidad y votó en contra de una transaccional firmada por upyd

que pedían entre otras cuestiones más lucha contra el fraude fiscal y la recuperación del impuesto

obviamente no hemos iniciado nosotros todos los debates ni mucho menos pero me parece justo recordar que ya por el año dos mil nueve algunos pedíamos cambios fiscales y en concreto una fiscalidad más progresiva algunos pedíamos la recuperación del impuesto sobre el patrimonio en euskadi algunos criticábamos y algunos criticábamos la deducción generalizada de los cuatrocientos euros del señor zapatero algunos criticábamos la reducción del impuesto de sociedades llevada a cabo por zapatero y que supuso nada menos que casi nueve mil millónes de euros menos para las arcas

o el cheque bebe para todo ciudadano independientemente de su nivel de renta o las sociedades de promoción de empresas hoy finalmente desaparecidas

el grupo socialista entonces se oponía junto con el resto de grupos parlamentarios de esta cámara a iniciar ese debate y a impulsar estas reformas

son asumidas por un mayor número de grupos parlamentarios

ya en diciembre del año dos mil nueve pedíamos un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y esto

y al partido nacionalista vasco pero también frente al partido socialista de euskadi que hoy recuerda

su falta de voluntad política para impulsar durante los dos últimos años cambios fiscales en euskadi mientras olvida su responsabilidad previa

el partido socialista de euskadi carece de responsabilidad carece de pasado como si nunca hubieran gobernado

ustedes mantenían y defendían la misma fiscalidad que el partido nacionalista vasco critican critican hoy con razón pero hace tres años hace algo más de tres años compartían el mismo modelo fiscal digo esto por recordar pues la memoria de algunos parece selectiva y porque me parece justo hacerlo

defendiendo determinadas propuestas algunas de las cuales ya casi nadie cuestiona es obvio que si estas medidas y otras muchas se hubieran aprobado

o en dos mil once mejor habríamos enfrentado la crisis durante esos años y los siguientes del mismo modo que es una obviedad

y el partido popular hubieran tenido otra actitud

el año pasado este año podríamos hacer unos presupuestos mejores con menos recortes sociales o sin recortes sociales por lo tanto las dos cosas son verdad señor lópez no solamente una de ellas las dos cosas son verdad

de memoria histórica avanzo para decir que en nuestra opinión y

es imposible debatir seriamente sobre la fiscalidad en euskadi sin al menos mencionar y en nuestro caso criticar el disparatado modelo

modelo que condiciona no solamente las políticas fiscales que pudieran aplicarse sino toda la política y todas las decisiones políticas en el país vasco el modelo foralista no es tan intangible es bastante tangible y nos perjudica a todos los ciudadanos gravemente es

como euskadi de apenas dos millónes de habitantes tenga cuatro parlamentos y tres haciendas forales al margen del control del parlamento vasco es un absurdo evidente que una comunidad como euskadi tenga

tres haciendas tres políticas fiscales distintas es un disparate que los ciudadanos vascos paguemos distintos tributos en función del territorio histórico donde vivamos carece de sentido es un absurdo por lo tanto del mismo modo por cierto que que un ciudadano español pague distintos tributos en función de la parte de españa donde viva defendiendo los mismos principios es

que no aprueba sus normas fiscales en su parlamento lo hace formalmente a través de tres votaciones en cada una de las tres juntas provinciales podría hacerlo quizás a través de la aplicación de la mencionada ley vasca tres barra ochenta y nueve de treinta de mayo en la que se especifica que el parlamento vasco tiene competencias fiscales y puede fijar

no se ha hecho en todo caso nosotros volvemos a defender que las competencias fiscales residan en este parlamento sin menos cabo de que efectivamente

consideramos que debamos avanzar hacia una sola política fiscal no ya en españa sino en el conjunto de europa eso debería ser el futuro

este sistema no solo rompe la igualdad sino que el hecho de que existan tres políticas fiscales diferentes nos impide alcanzar la mejor política fiscal posible porque es habitual que ocurra y así ha ocurrido históricamente que cada territorio histórico utilice

digamos que para hacer competencia al resto de territorios históricos o a las comunidades autónomas vecinas y esto ha impedido y sigue impidiendo alcanzar la mejor política fiscal posible y provoca desarmonización fiscal y provoca por lo tanto evidente desigualdad

y coordinar las políticas fiscales tenemos el órgano de coordinación tributaria cuyo modo de funcionamiento es

para todos nosotros algo absolutamente opaco este órgano

cuanto antes debemos modernizarnos y ese nuevo modelo que nosotros propondríamos órganos de esta naturaleza desaparecerían además

en nuestra comunidad lo normal sería que su cálculo fuera absolutamente claro sin embargo ocurre todo lo contrario

y crecen las voces de quienes señalan que el cálculo del cupo supone una sobrefinanciación para los ciudadanos vascos espero que los progresistas alcen la voz ante

para nadie pero tampoco para nosotros en todo caso que no se calcula sino que más bien se negocia políticamente como históricamente ha ocurrido por tanto tenemos un sistema opaco confuso

que provoca disfunciones y duplicidades y que evita que tengamos la mejor política fiscal posible y en euskadi es obvio que a día de hoy no tenemos ni de lejos

que en el resto de europa la presión fiscal es claramente inferior a la media de la unión europea y por lo tanto

somos partidarios de que puedan incrementarse determinados somos partidarios de que puedan incrementarse determinados impuestos pero para garantizar el estado del bienestar la sanidad la educación

sociales para defender más igualdad para defender la justicia social para defender la distribución de la riqueza pero no para pagar

o para privatizar determinados aspectos de nuestra administración no para soportar un modelo foral absolutamente insostenible no para sostener el elefantiásico modelo foral actual no para sostener un gasto institucional a todas luces excesivo y desde luego priorizando la lucha contra el fraude fiscal nosotros en todo caso queremos y proponemos cambiar el actual modelo foralista racionalizarlo modernizarlo y democratizarlo en fin o directamente hacerlo desaparecer por ser más

un sistema de riesgos como el concierto económico ni un cupo opaco ni un entramado institucional que provoca ineficiencias y duplicidades

ni tres políticas fiscales distintas que provocan desigualdad ni cuatro parlamentos ni tres diputaciones forales que hagan oposición al gobierno vasco

y en transparencia para servir mejor en definitiva a los ciudadanos nosotros proponemos por lo tanto que la política fiscal sea competencia del parlamento vasco evidentemente para modificar radicalmente este sistema tal como lo proponemos habría que modificar

o la ley de territorios históricos nosotros no tenemos miedo no pensamos que haya leyes sagradas ni la ley de territorios históricos

ni la constitución española todo puede cambiarse obviamente con el mayor consenso posible pero en todo caso nosotros décimos que sí

y mientras tanto es decir mientras no se alcanzan esos objetivos que upyd plantea pues obviamente plantear todas las modificaciones

y sabiendo el campo de juego foralista en el que nos movemos aunque no nos guste porque el propio terreno de juego el foral es un verdadero como decía antes para aplicar la mejor fiscalidad posible y atender de la mejor manera posible y de la manera más igualitaria posible y de la manera más justa posible a los ciudadanos no solamente porque estemos en situación de crisis estamos obligados a analizar casi permanentemente la política fiscal de modo que podamos

e impulsar la política fiscal más justo más progresista

que sirva para mantener el estado del bienestar tenemos que hacerlo continuamente y en este caso también debe servir para impulsar la actividad

sino todo lo contrario a proponer medidas concretas que deberían hacerse realidad cuanto antes efectivamente luego propondremos algunas en forma de proposiciones

hoy toca plantear por tanto propuestas que al menos puedan servir para acercar el indispensable acuerdo entre las distintas formaciones políticas

treinta años después seguimos necesitando un plan conjunto contra el fraude fiscal que haga disminuir el fraude y la elusión fiscal a niveles al menos soportables y el fraude fiscal hoy en euskadi absolutamente insoportable y esto hay que cambiarlo y no tenemos un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal como consecuencia de esta estructura pero también de la actitud boicoteadora y muy poco responsable de las diputaciones forales así como de la negativa permanente de los partidos foralistas aquí presentes y que no llegan al cincuenta por ciento de los parlamentarios no sé si el resto de partidos políticos

lo cierto es que en la práctica han venido siéndolo nosotros no lo somos lo hemos demostrado y proponemos por lo tanto llevar a la

reivindicamos la necesidad de articular un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal para el conjunto de euskadi que refuerce los mecanismos de colaboración

tributarias desde luego las estrecheces económicas y presupuestarias nos obligan a ello pero esta debería ser una lucha permanente e independiente de que vivamos o no en una crisis económica puesto que el fraude y la elusión fiscal atentan contra la igualdad de los ciudadanos y son consultas éticamente

el fraude fiscal perjudica la financiación de la administración fomenta la insolidaridad y la injusticia y distorsiona la actividad económica

reduce el estado del bienestar y el gasto social el fraude fiscal nos empobrece a más fraude fiscal más recortes sociales fraude fiscal menos recortes sociales a menos fraude fiscal más estado del bienestar a menos fraude fiscal más igualdad

a pesar de que las competencias en política fiscal y lucha contra el fraude corresponden a las diputaciones forales es necesario que se impulse por parte del gobierno vasco un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal algunas medidas para luchar contra el fraude se han impulsado en los últimos meses cierto es pero siguen siendo

por lo tanto un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal que contemplara al menos algunas de las siguientes medidas elaboración un plan de lucha contra el fraude fiscal con objetivos

y medibles incremento del número de inspectores y del número de inspecciones fiscales impulso de la formación continua de los inspectores fiscales reforzamiento y agilización de los mecanismos de colaboración coordinación transparencia e intercambio de información entre todas las administraciones tributarias

estableciendo sistemas de alarma mediante medios informáticos y estadísticos modificación de toda aquella normativa tributaria que posibilite el mantenimiento de regímenes especiales poco transparentes como son las sociedades de promoción de empresas o que faciliten el fraude el engaño o la fuga de ingresos fiscales

realización de campañas que promuevan la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sitúen el fraude como comportamiento inadmisible

anual y presentación en sede parlamentaria en esta sede de estudios sobre el fraude fiscal desde luego

una política fiscal basada en los principios de progresividad justicia y solidaridad que haga posible el principio general de que pague más quien más tiene

obviamente defendemos aquellas medidas de política fiscal dirigidas a favorecer el impulso de la actividad económica el crecimiento del empleo

y el sostenimiento del estado del bienestar defendemos gravar más a las rentas de capital hasta gravarlas del mismo modo que las rentas del trabajo es decir equiparar las rentas de capital a las rentas del trabajo defendemos iniciar al menos una reflexión acerca de determinadas deducciones lineales existentes

deducciones que no tienen en cuenta los ingresos de cada contribuyente familiar deducciones en definitiva claramente regresivas y muy poco progresistas defendemos un impuesto de sociedades armonizado para euskadi

y la revisión de muchas de las deducciones actualmente vigentes en este impuesto y lógicamente ofrecer un tratamiento fiscal diferenciado

obviamente rechazamos contundentemente todas las amnistías fiscales y en concreto la última impulsada por el gobierno central

sino también porque desincentivan la conciencia social y la solidaridad que implica contribuir con los impuestos a las cargas del estado del bienestar y al interés común rechazamos igualmente tratos privilegiados a determinados deportistas profesionales como luego plantearemos

propuestas de resolución seguimos defendiendo la supresión total del régimen de sociedades de promoción de empresas régimen especial poco transparente utilizado como coladero por algunos para pagar menos impuestos

durante largos años mientras ustedes en fin la mayoría de ustedes han venido gobernando porque todos ustedes

estas propuestas y en concreto algunas de las propuestas que ustedes mismos plantean hoy o que ha propuesto el propio señor lópez

mucho antes no se hizo y ahora estamos como estamos soportando

nuevos recortes sociales y desde luego defendemos la necesaria armonización del denominado impuesto sobre el patrimonio o renta

para el conjunto de euskadi en conclusión defendemos la reforma del modelo institucional y fiscal vasco para hacerlo más razonable

el traslado de las competencias fiscales al parlamento vasco una lucha prioritaria y mucho más intensa contra el fraude fiscal y una política fiscal

que la actual que garantice las políticas sociales y el estado del bienestar y que impida más recortes sociales una política fiscal por lo tanto para defender

más solidaridad más y mejor distribución de la riqueza una política fiscal que atienda más y mejor a los ciudadanos que menos tienen

se tenía que haber hecho mucho antes se tenía que haber hecho hace muchos años unos y otros

y las reformas fiscales necesarias nosotros esperamos que sea posible hacerlo ahora nada más y muchas gracias eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señor lópez nos ha traído un debate viejo

nos habla de un sistema fiscal injusto y hay que recordarle que tenemos el suyo el del partido socialista obrero español en españa y el del partido socialista de euskadi en el país vasco el que ustedes han aprobado

solo por recordarle que usted ha sido el lehendakari del gobierno vasco hasta hace escasamente un mes

y todo lo que usted nos ha dicho hoy aquí que hay que hacer es lo contrario de lo que han hecho estando en el gobierno en todos los gobiernos y de lo que siguen haciendo ustedes en las instituciones competentes para aprobar

y luego si quiere hablamos de las enmiendas que el partido socialista ha presentado por ejemplo en álava que es donde se aprueban los impuestos y las reformas fiscales

y hablamos de coordinación y armonización fiscal porque salir a esta tribuna a decir una cosa y hacer exactamente la contraria

hoy en las instituciones competentes para aprobar la reforma fiscal

yo no lo voy a calificar de ninguna forma el señor maneiro nos viene a hablar de que a él le sobran los territorios históricos y todo pero es que usted no sé de qué nos ha venido a hablar porque usted además es secretario general de ese partido supongo que después de oírle a usted aquí hoy

que retire las enmiendas que acaba de presentar usted en álava porque es lo contrario de lo que usted ha dicho aquí el sistema es injusto

yo no voy a defender la justeza del sistema fiscal todos los sistemas son mejorables

nos habla de los recortes yo no conozco a nadie que haya recortado la renta de garantía de ingresos al siete por ciento que no sea usted

a las pymes un punto que es la única propuesta fiscal concreta que le hemos oído no la ha planteado su partido en ninguna de las tres instituciones y ahora se están tramitando esas reformas fiscales nos dice usted que durante años en esta cámara se nos ha engañado y se nos ha dicho que es que aquí no había competencias fiscales le voy a recordar que nosotros la legislatura pasada estando usted en el gobierno

de ayuda a los emprendedores y nosotros teníamos allí un articulito que solo decía lo siguiente

presentaría propuestas fiscales y sabe qué dijo su gobierno

que era competencia de las diputaciones forales su gobierno

y evidentemente en la comisión arbitral hubo que retirar ese articulo fíjese lo que le estoy diciendo que nosotros decíamos que el gobierno vasco proponga

propuestas fiscales ni siquiera planteábamos cuáles tenían que ser ni ningún texto articulado

que no teníamos competencias para hacerlo nos habla de coordinación y armonización y nos va a traer usted un proyecto de ley de coordinación y armonización oiga

pero qué han hecho ustedes en gipuzkoa estando ustedes en el gobierno vasco ustedes han desarmonizado descoordinado y descoyuntado gipuzkoa el partido socialista de euskadi

yo le dije que llevaba cuatro meses esperando la propuesta fiscal del partido socialista y del gobierno socialista con el que me había reunido en el mes de noviembre

para llegar a un acuerdo y que no se produjeran esos desajustes que luego se produjeron hasta hoy hasta hoy seguimos esperando su propuesta para que no haya desarmonización pero si ustedes han desarmonizado

armonice su partido presente lo mismo en los tres territorios voten lo mismo en los tres territorios

y nos ha hablado del fraude que es el tema recurrente y del plan que tiene que ser conjunto

que la diputación de gipuzkoa accede directamente sobre cualquier guipuzcoano a cualquier bien que tenga en cualquier parte de españa

en navarra o en guadalajara apretando una tecla y la diputación de álava con cualquier contribuyente alavés

con cualquier contribuyente vizcaíno para eso que ustedes dicen no hace falta hacer ningún plan

y presenta su primera propuesta en álava es que álava

en ningún momento se dice que tiene que ser un plan ni con el gobierno vasco ni con las demás diputaciones sino que la administración tributaria elaborará anualmente un plan de lucha contra el fraude

encima les avisamos a los defraudadores a los posibles defraudadores a quienes se les va a investigar

una contribución a la lucha contra el fraude fantástica eso es lo que ustedes están tramitando hoy en las administraciones competentes para hacer la reforma fiscal

ordenara a su grupo en juntas de álava que retire todo

que estamos en febrero de dos mil trece

porque usted estaba planteando que como se caen los ingresos hay que hacer una reforma para

que nunca íbamos a tener los mismos ingresos fiscales

y mientras no hubiera más empresas pero por eso le tengo que decir que qué es lo que está pasando porque tenemos menos ingresos muy fácil lo sabemos todos porque cada vez pagamos menos

y menos empresas porque como le digo estamos en febrero de dos mil trece el cuarto trimestre el último de su gobierno el pib en la comunidad autónoma cayó el uno coma siete por ciento

el sector de la construcción el seis coma tres por ciento el sector de servicios el cero coma nueve por ciento y el sector primario creció pero claro de ese comen pocos

produjo que en dos mil doce el año pasado se recaudaran más de setecientos millónes de euros menos de los previstos menos

el año pasado después de subir el iva y después de subir todos los impuestos

y por qué se recaudo menos porque hay más paro y porque hay menos empresas

y tenemos un problema que ese sí es un problema de país porque aquí se puede hablar mucho de que hay que mantener el gasto social pero el gasto social solo se mantiene

pues evidentemente ni gasto social ni nada de nada el paro según el gobierno vasco

abandonó el mercado laboral por jubilación por desanimo o por abandono del territorio por eso tenemos

que es mayor aun que la tasa de actividad cada vez es menor y la perdida de población activa en dos mil doce ha sido del dos coma ocho por ciento es decir más de treinta y cinco mil personas que ya no van a trabajar

cada vez somos menos en todos los aspectos y no le voy a recordar que solo en el mes de enero pasado han cerrado

pues podemos subir el impuesto de sociedades todo lo que queramos pero si se van cerrando empresas recaudaremos menos y este es el debate real

no se caen porque hemos bajado los impuestos los hemos subido llevamos dos años subiendo todos los impuestos también en esta comunidad autónoma

pero como le decía cada vez pagamos menos menos gente el irpf y menos empresas en el impuesto de sociedades

aunque no cierren si no tienen beneficios usted le puede poner si quiere el ochenta por ciento del tipo que sobre cero es cero

subir impuestos en el papel nunca ha implicado que se recaude más dinero

y setecientos millónes de euros menos el año pasado y por lo tanto si tenemos un problema de pérdida de población activa de envejecimiento de la sociedad y cada vez con mayores gastos sociales nosotros entendemos y entendemos que cualquier persona razonable que le interese

es que las medidas fiscales tienen que ir a incentivar eso que haya más gente trabajando y que seamos más para poder pagar

el que vamos a tener dentro de cinco años que va a ser mucho mayor que el de ahora

y por ahí tiene que ir toda reforma fiscal que hagamos que se mantenga y se cree empleo y que

o que tengamos más hijos y seamos más porque es que cada vez somos menos para pagar a cada vez una población más envejecida

pues que no lo vea pero ese es el problema de este país y ese es el problema que tuvo su gobierno de falta de ingresos y ese es el problema que va a tener este gobierno de falta de ingresos y ese es el problema que van a tener todos los gobiernos de este país si no se toman las medidas que corrijan eso que es la base del problema que tenemos

que nosotros hoy subimos todos los impuestos hoy con efecto cuándo el uno de enero del año que viene mayor recaudación fiscal este año en el supuesto de que se produjera cero euros el problema que tiene este gobierno de dos mil doscientos millónes de euros

este año no se soluciona con ninguna subida de impuestos con efectos el año que viene por lo tanto

habrá que adecuar el gasto a los ingresos reales que tenemos y habrá que buscarlos a lo mejor en otro sitio cosa que por cierto su gobierno hasta la fecha no hizo

que este parlamento porque es que también nos dicen ustedes es que en este parlamento

cuatro preguntas en pleno siete interpelaciones tres mociones ocho proposiciones no de ley

sobre este tema sabe qué medidas fiscales adoptó su gobierno porque hubo una a propuesta de la antigua aralar que le instaba al gobierno vasco a que en sus competencias fiscales las ejercitase y yo solo recuerdo dos y le voy a decir una

en su primer presupuesto para el dos mil diez en ese que había que incrementar la deuda

en el que su gobierno propuso la congelación de las tasas y no voy a decir más

sí la bajada del tipo del impuesto sobre el juego del cinco al tres coma seis y le voy a decir cuál fue el argumento que nos dieron a nosotros cuando nosotros lo preguntamos en comisión de su consejero de hacienda para favorecer ese sector económico que en fin que no estaba pasando por un buen momento es decir fíjese usted

ustedes bajaron el tipo para favorecer a ese sector empresarial eso gobernando usted

eso es lo que usted ha hecho hace dos años aquí con los mismos problemas que ya teníamos hoy hoy agravados eso es lo que usted ha hecho en política fiscal desde este gobierno tenían ustedes más competencias

usen ustedes esas competencias que tenían y qué más y a este parlamento en todos esos debates

trajeron alguna medida algún planteamiento no por la prensa nos enterábamos que estudiaban el céntimo sanitario que estudiaban el recargo a la venta minorista de hidrocarburos que estudiaban recargos en otros aspectos pero ustedes aquí no trajeron nada

nos habla usted de que en el impuesto de sociedades la elusión fiscal pero si según ha llegado mariano rajoy al gobierno de españa ha tenido que cambiar el impuesto de sociedades y los beneficios fiscales

multinacionales tributaban cero cero si este año el gobierno de

solo por esa medida por quitar las bonificaciones que les dio el señor rodríguez zapatero a las grandes empresas

nos hace el discurso que nos dice esto es injusto la culpa es de los demás

lo que ustedes han hecho lo que ustedes han hecho nos dice es que las rentas de capital tributan distinto y menos que las de trabajo pero si lo hicieron ustedes pero si es su política fiscal lo hicieron

es que eso lo tenemos así hoy aquí porque ustedes lo aprobaron y nos dice que es injusto y nos echa la culpa a los demás

que las normas fiscales se aprueban con años de antelación para que tengan efectos que ninguna tiene efecto al día siguiente bueno sí la de la subida del iva si se quiere pero el resto no

es injusto claro y luego nos dice en cuanto al fraude

hay empresarios que defraudan sí claro y hay profesionales que defraudan sí claro y hay autónomos que sí claro

y hay beneficiarios de la renta de garantía de ingresos que defraudan también

y en el irpf también también claro

de todo hay pero en la lucha contra el fraude no nos vengan a decir que nosotros sí le voy a decir una cosa

es evidente que lo que hay que hacer es intentar acabar con todos los defraudadores que hay porque cuantos más seamos pagando más se recaudará

eso es evidente pero claro

se compra un piso en castro o en cádiz y la hacienda vizcaína alavesa o guipuzcoana no se entera

está muy equivocado eso ya existe hace muchos años por eso a algunos les pillan yo no sé qué concepto tienen ustedes de cómo funciona esto

no hay coordinación no hay información y no hay trasvase de datos

la hacienda navarra oiga con una tecla

y salen los datos del contribuyente en toda españa en toda españa así de fácil y sencillo lo que nosotros nunca hemos entendido de sus propuestas es para qué demonios la diputación de bizkaia necesita saber los datos de un contribuyente guipuzcoano

la diputación de gipuzkoa necesita saber los datos de un contribuyente de guadalajara o por qué la agencia tributaria española

o por qué el gobierno vasco tiene que tener los datos de todos cuando ni recauda ni inspecciona eso es lo que nunca hemos entendido por qué tenían ustedes ese empeño en que se produzca eso que evidentemente atenta también contra unas leyes suyas

yo hoy le he odio una propuesta el año pasado por estas fechas

nos quedamos a esperarlas y no las vimos porque no había ninguna propuesta concreta bueno este año usted aquí por lo menos ha hecho una

y que por ejemplo esa propuesta suya de bajar a las pymes un punto el impuesto de sociedades la planteen

a día de hoy no han planteado nada le voy a decir lo que han planteado

han planteado a los fondos de pensiones sacudirles quitar el mínimo exento de las rentas de capital esto en álava

que los empresarios en álava no declaren los ingresos debe ser una forma de lucha contra el fraude fiscal

todo el capítulo que regula los beneficios empresariales en un alarde de lucha contra el fraude fiscal

haya impuesto de sucesiones de padres e hijos en álava plantean y esto es curioso porque en álava han planteado una subida del catastro cuando álava tiene el catastro actualizado y sin embargo en bizkaia

los ayuntamientos del partido socialista se niegan a actualizarlo

y los de bildu pero hay que subir los impuestos a los ricos

aquí los de izquierdas tanto que le gusta a usted esto de la izquierda y la derecha los de izquierdas son los que en bizkaia plantean

a actualizar el catastro que lleva sin actualizar desde hace más de cuarenta años ahí donde pueden hacerlo desde las alcaldías

pese a que en eudel presuntamente estaban de acuerdo usted que nos dice que los impuesto indirectos

para todo el mundo da igual es que su progresividad yo no sé si la progresividad del partido socialista se mide en le deducción que pusieron de cuatrocientos euros al señor botín en la declaración de la renta

como sobraba el dinero esa es su progresividad

a nosotros no nos hable de progresividad ni nos vengan a dar lecciones aquí con esta historia de izquierdas derechas

que es que el que más gana paga más y además porque lo exige la constitución no es un invento socialista lo exige la constitución

las medidas del partido socialista nunca han ido en esa dirección sino en toda la contraria ustedes están proponiendo subir el

en función de la renta no lineal para todo el mundo

lineal para todo el mundo en impuesto de sociedades ustedes lo que están planteando no es nada de lo que usted ha dicho en ninguno de los tres territorios y del plan de inspección alavés pues ya le ha dicho

y lo que han planteado ustedes en impuesto de patrimonio en bizkaia poco o nada tiene que ver con lo que han planteado ustedes en gipuzkoa

pero poco o nada tiene que ver con lo que han planteado en álava y usted nos viene a hablar le vuelvo a repetir de coordinación y armonización empiecen por ustedes

por qué nunca recibimos una propuesta fiscal del partido socialista

porque no la tienen porque en cada territorio cada uno hace lo que le parece bien

diciéndonos a los demás que este parlamento tiene que armonizar y coordinar lo que el partido socialista

y descoordina sus propuestas

del fraude son nulas

de que todas perdón nulas no en álava plantean que sea la diputación de álava la que tenga su plan de inspección evidentemente como siempre

que estamos de acuerdo estamos en absoluto desacuerdo en que el plan de inspección se publique ni en ningún boletín ni en ningún sitio

no de avisarles con tiempo de que vamos a ir a por ustedes a ver si consiguen escaparse no tiene ningún sentido

a lo mejor sobre el papel queda muy bonito pero si de verdad les preocupa el fraude fiscal

así que si de verdad se cree señor lópez el discurso que nos ha hecho aquí lo que tiene que hacer

en las tres provincias es decirles que voten en contra de lo que han presentado nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna jarraian

eta bizkor bat erdiestea gure helburua baldin bada porque lo primero que debemos preguntarnos es qué país queremos qué sociedad queremos qué servicios públicos queremos en definitiva

para nuestros ciudadanos y ciudadanas y a partir de ahí construiremos entre todos un sistema fiscal

un sistema fiscal que lo sustente un sistema progresivo equitativo y solidario la presión fiscal

fue del veintinueve coma tres por ciento del producto interior bruto en el mismo año en dinamarca era del cuarenta y ocho por ciento en suecia de casi el cuarenta y siete por ciento en rumania del veintisiete por ciento y en bulgaria de casi el veintinueve por ciento

nosotros lo tenemos bien claro guretzat

jarraikiz en los últimos años hemos asistido en toda europa y en especial en el estado español y aquí en euskal herria a un ataque

los impuestos indirectos sobre los directos y esta eliminación de la progresividad de la fiscalidad está acabando con la posibilidad de la redistribución

que es uno de los objetivos fundamentales de cualquier política fiscal aldaketa guzti horien ondorioz presio fiskala

ejemplos de estas reformas tributarias que han contribuido a la reducción de la recaudación hay muchos la dualidad es decir

tuvieran su propia tasa y no se sumaran a los rendimientos del trabajo y así a la escala progresiva

en los dividendos la deducción de los cuatrocientos euros la reducción del tipo marginal máximo la reducción del impuesto de sociedades y la eliminación del impuesto de patrimonio y podemos ver en los datos de recaudación también el efecto directo

así las reformas del impuesto de sociedades supusieron una reducción directa de recaudación del doce por ciento la del noventa y seis del veinticinco por ciento la del dos mil siete y en el caso del irpf tenemos un trece por ciento en el noventa y nueve un cinco por ciento en el dos mil uno un ocho por ciento en el dos mil tres

directos no efectos por reducción de actividades económicas efectos directos

por las reducciones aplicadas en los diferentes impuestos beraz

proponemos la tasa sobre las transacciones financieras las transacciones

cada vez son más y sin límite alguno en esta economía mundial

además de las transacciones por motivos económicos o sociales

exclusivamente especulativos sin que generen valor añadido ninguno

para mover capitales a los diversos paraísos fiscales creemos que la implantación de una tasa de este tipo

nos haría aumentar la conciencia social sobre el reparto mundial de la riqueza y que el principal carácter de la economía no es la especulación sino la mejora

la comisión europea presentaba su propuesta para un impuesto de este tipo veremos en qué se concreta dicha propuesta y cómo podremos implantarla en nuestro país proponemos también

el objetivo instaurar una nueva fiscalidad basada en hechos imponibles ambientales para la internalización de los costes externos ambientales

de las conductas que producen impacto ambiental y que anime a la responsabilidad social de las personas tanto físicas como jurídicas se trataría en definitiva de una imposición de carácter finalista para financiar la recuperación

pasivos ambientales existentes en euskal herria en forma de suelos contaminados ríos alterados calidad degradada del aire biodiversidad amenazada o paisaje

si el sistema institucional vasco es bueno que nos ha situado entre los mejores indicadores socioeconómicos europeos y seguiremos mejorando

qué país queremos qué modelo de país queremos pues le respondo con la misma respuesta que le he dado al señor maneiro queremos un país cuyos indicadores socioeconómicos sigan estando entre los mejores de europa un país que siga siendo que siga nuestro modelo vasco de desarrollo humano sostenible

es referente en muchos lugares fuera incluso de nuestras propias fronteras orain dela bederatzi hilabete eskas

ustedes dicen que han estado durante tres años solos que durante muchísimo tiempo han estado intentando hacer este debate que ha sido el partido nacionalista vasco quien no ha querido dar aire a este gobierno

que ustedes han gobernado la legislatura anterior que ustedes han tenido un acuerdo de bases con el partido popular

acuerdo de legislatura en el que ni tan siquiera se mencionaba nada al respecto

si ustedes hicieron ese acuerdo con un mínimo de responsabilidad entendemos que algo que para ustedes es tan prioritario debiera

dicen que les debemos tres años y nosotros sinceramente no les debemos nada le recuerdo que nosotros no liderábamos

y no nos pueden hacer responsables de su inacción de lo que no fueron capaces de hacer porque la culpa de todo

no nos pueden responsabilizar al pnv de no haber ejercido el liderazgo para lograr acuerdos es más nuestra responsabilidad política

en contra de sus presupuestos a pesar de que siendo múltiples las enmiendas que desde nuestro grupo parlamentario se presentaban ustedes no las aprobaban ha hablado también de que el discurso de la fiscalidad

terminar en este sentido diciendo que ustedes empiezan a hablar sobre fiscalidad a partir de las elecciones generales del dos mil once cuando rubalcaba

que por cierto nosotros y haber quién no

empiezan a hablar de esto saiatuko gara gaur

eta zelan azalduko dugu zergatik llevamos un tiempo asistiendo a un debate tributario donde se pone el foco

de la comunidad autónoma para ajustar los gastos previstos a una nueva necesidad de ingresos y los tributos tienen evidentemente

públicos pero no es su función determinante los tributos los impuestos deben hacer frente a tres consideraciones previas y en esto coincidimos con usted y con su posicionamiento señor lópez la progresividad

la incentivación de la actividad económica como motor fundamental de la generación de empleo y recursos y en un tercer ámbito la necesidad de aprovisionamiento

para atender a los servicios esenciales nuestra prioridad es la recuperación económica y la generación de empleo el pib de la comunidad autónoma vasca de dos mil doce ha caído un uno coma dos por ciento se estima que

un uno coma uno por ciento para dos mil catorce se espera un crecimiento del uno coma dos por ciento la cifra total de personas en paro el último trimestre de dos mil doce es de ciento treinta mil doscientos personas un doce coma ocho por ciento se estima que este dos mil trece en euskadi

perderán su empleo llegando a tasas de desempleo que alcanzarán el trece coma cinco por ciento de la población activa en el caso de la juventud

es francamente alarmante superando ampliamente el treinta por ciento del colectivo los datos que ayer presentó confebask son

han desaparecido desde dos mil ocho seiscientos treinta y nueve sociedades han cerrado

este último mes es imprescindible que adoptemos medidas que incentiven la economía y la recuperación económica estabilidad certeza continuidad no se puede estar continuamente modificando el marco por eso les proponemos un pacto fiscal entre todos los partidos políticos que tenga continuidad que dé certeza seguridad y confianza

la fiscalidad requiere certidumbre y el tejido social y empresarial también mundu mailako krisi ekonomikoaren seigarren urtean sartu gara

en cuanto a los ámbitos que contiene el documento presentado por un lado aborda medidas a adoptar en la coordinación de la lucha contra el fraude

y del impuesto de sociedades incluye además otras figuras tributarias que deberían ser concertadas y finalmente hace una mención a la necesidad de armonizar algunas normativa ya aprobadas guretzat pinedo andrea

ez da aitzakia guretzat guztiz beharrezkoa da en los últimos años se han producido algunas iniciativas aisladas

sin consenso básico han provocado desarmonizaciones entre territorios consecuencia de ello el principio de igualdad ha quedado maltrecho por ello consideramos importante armonizar normativas

debemos respetar la singularidad de cada territorio se trata de un documento base en el que se identifican las partes sustanciales de cada impuesto deducciones tipo regímenes especiales se hace una disección

de cada tributo para analizar las consecuencias que pudieran tener determinadas alteraciones

la lucha contra el fraude ha sido un objetivo prioritario del pnv tanto desde el ejercicio de responsabilidad institucional como desde la oposición zirrikituak pinedo andrea

zarratuta dagoz un proceso donde se ha ido mejorando y donde debemos continuar perfeccionando sería bueno que cada ámbito competente desarrollará una normativa específica que abordara una serie de medidas en cada territorio que incentivaran la persecución del fraude la lucha contra el fraude fiscal es competencia exclusiva de las diputaciones forales nosotros consideramos que en este ámbito debemos regirnos por el principio de subsidiariedad

más cercana a la ciudadanía una de las prioridades de las haciendas forales es combatir el fraude fiscal las diputaciones forales tienen planes de lucha contra el fraude fiscal se están tramitando normas forales con medidas antifraude en bizkaia

ha ido a comisión de juntas generales hay una intensa coordinación entre las tres diputaciones el gobierno vasco el gobierno de navarra

durante el dos mil once fíjense en la hacienda vizcaína se han recibido cuarenta y nueve millónes de datos durante un año

dieciséis informes de presuntos delitos trasladados al ministerio fiscal desde el dos mil tres al dos mil once bajo el mandato de josé luís bilbao

y más de un centenar de informes de presunto delito fiscal se han enviado a la fiscalía hay que ensalzar y valorar lo que se hace y se hace bien

hay que seguir mejorando en la lucha contra el fraude fiscal

que la administración más cercana a la ciudadanía es más eficiente iruzur fiskalaren aurkako politika dela eta

esate baterako se ha hablado aquí de planes de inspección conjunta y sí me gustaría decirles

el modelo de plan de inspección conjunta se corresponde con una situación del concierto en la que la competencia de inspección de los contribuyentes

sí en algunos era compartida pero se cambió de modelo el cambio de modelo

a una de las administraciones en exclusiva y el reparto del resultado de la inspección entre las administraciones representa un cambio en el modelo cada administración establece sus planes de inspección

en función de sus propios planes las cinco haciendas con competencia tributaria del estado tienen acuerdos de intercambio de información entre ellas

a aquel que tiene competencia respecto a cada contribuyente

se reparte entre cada administración por los puntos de conexión fijados en el concierto y en el convenio a esa administración competente

la información existente de cada uno de sus contribuyentes es importante señalar que la acción inspectora se realiza sobre ejercicios cerrados por lo tanto la necesidad de acceso no existe ya que lo importante es que se tenga la seguridad de haber recibido la información cosa que se produce en el modelo actual

en línea no garantiza además existe una amplia red de convenios para recibir y suministrar información entre administraciones y con entidades colaboradoras y se ha hecho referencia a la ley de armonización en relación con la interconexión y quiero leerles lo que dice ese artículo el artículo dice exactamente las diputaciones forales de los tres territorios

técnica necesaria intercomunicación técnica cosa que ya se está haciendo gaur egun

adibidez en el caso de la renta lo que se pretende es

al sistema sin embargo en el caso del impuesto de sociedades lo que se pretende es hacer más efectivo el impuesto que contribuya

y para la creación de empleo que permita a las empresas tener un ámbito de competitividad en un mercado cada vez más tasado

garapena eta berrikuntza babesteko ekimenak en cuanto a la

karga berezia estatu mailako jokoaren gaineko zerga la actualización del concierto económico es un tema prioritario ha habido modificaciones en la fiscalidad porque se han puesto en vigor nuevos impuestos que deben ser incluidos en el concierto para que así

abordar la reforma integral del irpf y de sociedades y el resto de modificaciones

hablamos de una normativa fiscal que debiera aprobarse en el año dos mil trece

al dos mil catorce nork eta non el pnv en la ronda de contactos previa

hizo un planteamiento abierto de pacto fiscal a todos los partidos con representación parlamentaria es probable que sea una tarea complicada porque las distintas formaciones tenemos diferencias sustanciales

pero también tenemos y muchos puntos de encuentro por ello debemos esforzarnos por responsabilidad política y debemos esforzarnos

las circunstancias y el momento que toca la realidad institucional vasca es por todos conocida tres diputaciones gobernadas cada uno por un partido político diferente

por ejemplo no están en ninguna de ellas entendemos que es razonable y necesario un acuerdo político previo trabajado con calma

de amplio espectro será trasladado al órgano de coordinación tributaria para su validación por este órgano técnico para posteriormente ser tramitada

que en este caso son los órganos forales las diputaciones y las juntas generales queda claro pues que se pretende abordar una reforma global

del conjunto de la arquitectura tributaria básica no parches ni medias propuestas se pretende hacer un repaso general

y de nuestras necesidades evidentemente no existe un único modelo de trabajo a seguir este que eaj pnv les propone es uno proponemos abordar la reforma de manera sistemática y no

les planteamos un pacto fiscal entre diferentes partidos políticos e instituciones competentes la fiscalidad necesita certidumbre y para este objetivo las alianzas son imprescindibles cuantos más nos aliemos mejor más competitivos seremos

si no cooperamos si no colaboramos necesitamos ser competitivos porque esa es nuestra oportunidad y la reforma fiscal integral puede ayudarnos a ello eaj pnvtik proposatzen dugun

apostamos firmemente por el diálogo en la búsqueda del acuerdo y el diálogo exige que todos y todas en alguna medida

nosotras y nosotros estamos dispuestos a ello eskerrik asko